y qué es lo que va a decir usted si no lo que acaba de decir y con lo que usted ha terminado lo que dicen todos los gobiernos todos los años cuando presentan

que estos son los mejores presupuestos posibles que se ocupan efectivamente de defender el estado del bienestar la sanidad y la educación que no hay nada que sobre vamos todos por el buen camino esto es lo que básicamente dice usted lo que han dicho todos los gobiernos de las últimas décadas siempre en cualquier lugar

el proyecto de presupuestos del ejercicio dos mil trece plagado de recortes y ajustes misma cosa dijo que eran los mejores presupuestos posibles y eran los presupuestos que iban a sacarnos de la crisis que iban a crear empleo estable y que gracias a ellos se iba a acabar con el desempleo y el paro es decir lo que dicen todos los gobiernos yo antes que nada también quería recordarle

o bien con los presupuestos de dos mil trece o bien con los presupuestos de dos mil doce que nosotros votamos en contra de los presupuestos del año dos mil doce y también incluso del ejercicio dos mil once y que presentamos una enmienda a la totalidad a los presupuestos planteados el dos mil trece es decir que no nos valen tampoco las cantidades señaladas y recogidas en esos proyectos de presupuestos ni del dos mil doce ni del dos mil once proyecto de presupuestos que criticamos porque incluían también recorte sociales que este último proyecto consolida esto para empezar con lo cual

tratado de acercarse en algún caso concreto a las partidas presupuestarias recogidas en el ejercicio dos mil doce a nosotros obviamente no nos vale evidentemente usted ha ido tratando de refutar

de upyd y creo que no nos vamos a poner de acuerdo nunca es evidente es decir nosotros mantenemos todo lo que hemos señalado en esa enmienda a la totalidad y seguramente ustedes mantienen todo lo que han recogido en este proyecto de presupuestos es que es cuestión de prioridades

las consideran ustedes suficientes y nosotros no la renta de garantía de ingresos las ayudas de emergencia social lo que se destina a las becas

lo que se destina a la salud lo que se destina al trilingüismo

lo que se destina a innovación todo esto que está ahí recogido a ustedes les parece suficiente a nosotros no nos parece en absoluto suficiente no nos parecían suficientes las cantidades del ejercicio dos mil doce estas todavía menos

imposible ustedes consideran que son correctas las cantidades que ustedes plantean

que si se impulsan determinadas reformas tendríamos más recursos para destinar a esto más recursos y que además teniendo los recursos de los que disponemos también se podrían marcar otras prioridades efectivamente

las consideran ustedes imprescindibles y nosotros no pero es que no hay margen posible de acuerdo representamos cosas distintas queremos cosas distintas

ustedes consideran imprescindibles el presupuesto de e i te be ustedes lo consideran apropiado lo que se destina este año y todos los años anteriores

etcétera y todo así y nosotros pensamos que no pensamos que son cantidades excesivas en algún caso excesivamente voluminosas

recogido en esa enmienda a la totalidad ya digo tenemos

políticas diferentes la fiscalidad evidentemente ya sé que se han impulsado determinadas y distintas reformas fiscales en los últimos años la más profunda

ustedes consideraban ya antes que no era necesaria esa reforma fiscal nosotros pensábamos que sí y que incluso esta se queda corta a ustedes les parece correcto a nosotros no nos recuerdan que efectivamente las competencias fiscales residen en las juntas generales de los territorios históricos y nosotros tenemos que volver a plantear que nuestra opinión sería

que las competencias fiscales residieran en este parlamento si tan positivo es una política fiscal que se coordine y que sea lo más igualitaria posible para qué queremos que las competencias fiscales residan en las juntas generales para nada y efectivamente

contra el fraude fiscal ustedes consideran que lo que se hace es suficiente de la misma forma que ustedes consideraban que lo que se hacía hace dos tres y cuatro años

han aceptado algunas propuestas concretas de algunos partidos políticos como la puesta en marcha de un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal antes decían que no era necesario

incluso con lo que se propone para luchar contra el fraude fiscal no es en absoluto necesario que las competencias están en las juntas generales correcto nosotros le pasamos un documento al señor consejero

defender en el órgano de coordinación tributaria una serie de propuestas concretas de lucha contra el fraude el consejero nos dijo que ni siquiera se comprometía a defenderlas

ustedes siempre piensan que no ya digo hace tres años pensaban ustedes que con lo que se hacía entonces era suficiente y ahora resulta que ustedes dicen que se hace más que entonces en qué quedamos que era suficiente con lo que se hacía o que no era suficiente nosotros pensamos que no era suficiente y que lo que se hace ahora sigue sin ser suficiente

o el entramado institucional que nosotros queremos reformar radicalmente profundamente

de diálogo pensamos cosas opuestas o el sector público societario que ustedes durante largos años han defendido que no había que tocar y ahora plantean un plan para el redimensionamiento y la racionalización del sector público societario pero para qué plantean un plan para el redimensionamiento si consideran que el sector público societario no está dimensionado o no está mejor dicho

si no está sobredimensionado para qué presenta el señor consejero un plan para el redimensionamiento pues para disimular para engañar a unos cuantos para hacer como que se hace algo

es claramente insuficiente a ustedes todo esto que se ha hecho lo poco que se ha hecho o la nada que se ha hecho les parece bien a nosotros nos parece que estas reformas políticas son absolutamente imprescindibles fiscalidad

lucha contra el fraude fiscal reforma del entramado institucional redimensionamiento profundo del sector público societario algo se han movido en esta dirección

casi siempre para intentar engañar a depende quién

algo cuando no lo hacen todo esto es indispensable hacerlo y evidentemente tenemos prioridades distintas de inversión y de gasto como he señalado antes

habría que impulsar todas estas reformas para tener más recursos y destinar esos recursos no a mantener instituciones inútiles o entes superfluos sino al estado del bienestar educación sanidad protección social

productivas nos da la sensación que el gobierno está más bien esperando a que pase el temporal

distintas a lo que se ha hecho en los últimos años no se hace no se quiere hacer para defender

para no perjudicarse a sí mismos por eso no se quiere hacer todo lo que nosotros planteamos en esa enmienda que lo repetimos todos los años y lo planteamos en distintos debates en este parlamento decía el consejero que la economía ha tocado fondo

fondo las ideas de los principales partidos políticos la pregunta es si hay vida inteligente en el gobierno

para hacer cosas novedosas respecto a lo que ya se ha hecho o ustedes únicamente se conforman con decir

o esta es la realidad que también ha dicho hoy el consejero esta es la realidad un gobierno yo creo que no puede decir esta es la realidad la realidad depende de todos nosotros la realidad se puede cambiar no vamos a hacer lo mismo que se ha hecho todos los años porque la situación no mejora por lo tanto es

y el gobierno si pueden hacer algo para cambiar esta realidad o basta con esperar acontecimientos nosotros no queremos esperar acontecimientos sino que queremos utilizar la política para cambiar las cosas y para mejorar la vida

radicales distintas a todo lo que ustedes plantean ya digo que un gobierno no está solo para cuadrar las cuentas y desde luego es bueno

pero sobre todo es bueno y es positivo que tengamos los mejores presupuestos posibles y estos no lo son en absoluto y que este gobierno y todos los partidos políticos juntos impulsáramos determinadas reformas que siguen siendo imprescindibles en euskadi y esto no se está haciendo en absoluto y por lo tanto

yo creo que el gobierno no puede pretender únicamente esperar

impulsando políticas distintas impulsando reformas impulsando algunas de las ideas que nosotros planteamos en esa enmienda a la totalidad no proponemos ninguna ilegalidad no proponemos que kutxabank aporte seiscientos millónes de euros o doscientos no proponemos que el tav o lo que se destina al tav

no proponemos ningún tipo de trampa ni ninguna ilegalidad creo que lo que proponemos es perfectamente coherente y perfectamente posible de llevar a cabo en fin

y los partidos políticos que van a apoyar este proyecto de presupuestos no quieren hacer en absoluto nosotros seguiremos defendiendo todo esto que hemos venido defendiendo en los últimos tiempos

un gobierno no solo está para cuadrar las cuentas como dice usted un gobierno está para cuadrar las cuentas y para hacer política pensando en la ciudadanía vasca en este caso en el caso del gobierno vasco no pensando en utilizar a euskadi como cebo perfecto

con esto para eso está un gobierno para

por eso el gobierno vasco ha presentado el proyecto de presupuestos que ha presentado haciendo un esfuerzo enorme en una situación

siguiendo los ejes y los que le he comentado anteriormente

gastu soziala indartzea eta ekonomia indarberritzea enplegua sortzeko apelaba usted a la inteligencia y apelo a su inteligencia usted hablaba de ir por el buen camino sea sincero usted cree que no vamos por el buen camino

que la política gubernamental que la política de este gobierno que los proyectos presentados por este gobierno no son buenos para la ciudadanía vasca sea sincero y apelo a su inteligencia otra cosa es la utilización política que usted haga de esto con ese catecismo político que tiene upyd con esos mantras y

que en un ejercicio de sinceridad que en un ejercicio de inteligencia usted sea capaz de decir que el proyecto de presupuestos presentado

que va por el buen camino usted decía y en eso estamos de acuerdo que tenemos poco poco prácticamente nulo espacio para el encuentro en lo que no estoy de acuerdo es en que dice usted que como pensamos distinto

eso es un error nosotros consideramos que hay que dialogar y le recomendamos esa práctica dialogar es muy bueno a pesar de que sepamos que quien está enfrente piensa radicalmente distinto que nosotros

berba egiteko que para el diálogo el partido nacionalista vasco siempre estará dispuesto con usted y con todos independientemente

muchas gracias señora presidenta es evidente que la postura de nuestro grupo lo conocía toda la cámara

el acuerdo al que nosotros llegamos con el gobierno vasco es evidente que este presupuesto que se ha presentado no es el nuestro no lo apoyamos tampoco su devolución no renunciamos a ninguna de nuestras ideas o de nuestros planteamientos y de ahí nuestras seiscientos enmiendas parciales

y sin embargo nosotros pensamos que es malo sería malo que siguiéramos dos años seguidos en plena crisis económica y con el desempleo creciente de seguir dos años seguidos iba a decir con un presupuesto prorrogado que contempla menos ingresos

presupuesto del que trae causa que sería el del año dos mil doce y me intentaré explicar porque es evidente que como tiene muchos menos ingresos

y al final queda al margen del control de la propia cámara el que

dónde se está recortando esos menores ingresos que en estos momentos tiene el gobierno y por lo tanto nosotros entendemos que es bueno que nosotros el parlamento vasco y todos los ciudadanos

exactamente cómo se ajusta el presupuesto y nosotros hemos hecho el acuerdo desde la responsabilidad que tenemos de saber que el gobierno vasco no dispone de dinero aquí todo el mundo hemos estado oyendo toda la mañana

pero nadie dice de donde sale el dinero y nosotros sí creemos que se puede sacar más dinero lo mismo que hicimos en el pacto fiscal que nuestras propuestas iban para mejorar

la fiscalidad de los autónomos la fiscalidad de los emprendedores

empleo es decir beneficiaba a empresas no a empresarios o trabajadores a todos en su conjunto

de intentar mantener y crear empleo porque nosotros hace ya muchos años cuando otros planteaban el reparto del trabajo nosotros decíamos que la mejor política social era la creación de empleo y por lo tanto seguimos manteniéndolo pero es que además financieramente es la más rentable

cobrando ayudas sociales pues las cuentas saldrán mucho mejor y por lo tanto en este acuerdo nosotros hemos puesto digamos

el dedo o nuestra mira en la ejecución de un presupuesto que evidentemente carece de margen de maniobra y cuando se dice que de dónde se puede sacar dinero nosotros sí entendemos que se puede sacar dinero pero claro es una cosa que este gobierno

no lo puede hacer en un año ni en dos pero en tres años sí que lo podría conseguir si este gobierno o cualquier otro gobierno no se tuviera que gastar

y pudiera destinar esos ochocientos millónes a otras cosas probablemente nos llegaría para todo y por lo tanto nosotros cuando aquí algunos plantean

realistas y pisamos el suelo como decía algún portavoz parlamentario

intentamos y consideramos que es bueno para el gobierno vasco es que esa deuda vaya disminuyendo y cuanto más disminuya y cuanto menos haya que pagar de la cuenta de la deuda más dinero podrá disponer el gobierno vasco en la ejecución de este ejercicio y en los siguientes para dedicarlo a políticas

esa es nuestra apuesta disponer de más dinero eso solo se hace ahorrando y es evidente que todos los grupos no nos vamos a poner de acuerdo en qué partidas ahorrarían unos y otros pero si nos ponemos

pues a lo mejor resulta que conseguimos

cuanto antes y no pasar en el dos mil doce a pagar doscientos millónes de euros en el dos mil trece cuatrocientos en el dos mil catorce ochocientos

es evidentemente controlar el gasto de la deuda y ese es nuestro acuerdo por eso nosotros hemos firmado el pacto que hemos firmado que es un pacto de ejecución presupuestaria y lo que nosotros esperamos ver de este gobierno es que además de cumplir las leyes

los socialistas no hemos apoyado la devolución de estos presupuestos aunque no son los nuestros pero valoramos las mejoras sustanciales que por impulso del partido socialista se han introducido en el mismo valoramos la rectificación del lehendakari

para entender que no se puede gobernar en minoría y que las políticas de austeridad a ultranza no son viables y valoramos también que a iniciativa de los socialistas el gobierno vasco y su partido hayan recorrido con nosotros

por eso hoy estamos en condiciones de posibilitar que el año próximo contemos con unos presupuestos que son desde luego

de los que ayer tuvimos que rechazar y adoptamos esa postura por las mismas razones por las que presentamos nuestra enmienda de totalidad a las cuentas públicas anteriores

entonces dijimos que era posible aumentar los ingresos en casi novecientos millónes de euros tanto por vía tributaria como por margen real de déficit y hoy tenemos unos presupuestos con novecientos millónes de euros más

la educación la investigación y las políticas sociales es decir

el tronco central del anterior gobierno dijimos que eran posibles otros presupuestos orientados al crecimiento y a la lucha contra la crisis y los que hoy tenemos sobre la mesa empezarán a abordar un plan trianual de incentivación económica y empleo

millónes de euros dijimos que había que compensar a pensionistas y a los sectores más vulnerables de la sociedad por el copago de las medicinas y hoy esas compensaciones

y hemos dicho también con posterioridad que pelearíamos para que se recogiesen otras mejoras en infraestructuras sanitarias de transportes de educación

o de empleo en zonas desfavorecidas y hoy tenemos presentadas enmiendas parciales que serán tramitadas con estos criterios y a la vista queda que había alternativas reales a lo que se propuso en el anterior presupuesto

afectaban al gasto social los que recortaban a más de la mitad el programa de empleo o reducían drásticamente los programas destinados a competitividad innovación

hay que reconocer que ha habido un cambio de rumbo que celebramos porque ya nadie habla de subir tasas académicas o de servicios públicos esenciales como alternativa

que nos dote de recursos para acometer las políticas de bienestar y ya ningún miembro de este gobierno opone las personas a las inversiones necesarias para avanzar

de que no podemos gastar lo que no podemos pagar porque ahora lo que nos planteamos es qué estado de bienestar queremos

lo vamos a sostener ya nadie defiende la política de recortes sociales porque el gobierno vasco ha tenido el acierto de hacer su propia enmienda a la totalidad a las cuentas públicas que nos presentó hace unos meses y ya nadie defiende por tanto los criterios austericidas del gobierno de rajoy que son los que aparecían en el anterior proyecto

y lo hacemos también por compromiso con un país que no se puede permitir el lujo de esperar entre otras cosas a que el partido de garitano ponga en marcha la revolución pendiente que parece que es incapaz de hacer allí donde gobierna ni puede esperar tampoco a que el partido de rosa díez

acabe en euskadi su santa cruzada contra los partidos viejos que son todos los que no son de upyd a pesar de que ellos tengan los lideres más viejos

la ciudadanía vasca nos exige realidades y menos soflamas

viene de este viejo partido el más antiguo de españa y el más antiguo de euskadi que se siente muy orgulloso de haber aportado a este país novecientos millónes de euros más

y de progreso y que va a seguir siendo y exigiendo al gobierno vasco y a su lehendakari que se pongan a partir de ya mismo a trabajar para recuperar el tiempo que hasta ahora hemos perdido

y empiecen a decidir las medidas necesarias para desarrollar el programa político que sustenta este presupuesto para que se ocupen de verdad de lo que realmente preocupa y mujeres vascas y no de lo que preocupa exclusivamente a los nacionalistas porque señor lehendakari

pero en ningún caso un cheque en blanco eskerrik asko pastor jauna gai zerrenda agortu denez osoko bilkurari